sí gracias presidenta señor oyarzabal no sé si otros seguramente sí seguramente otro sí pero nosotros no hemos pretendido hacer y no hemos hecho en ningún caso en ninguna caricatura de la ley

creo que hemos hecho un análisis riguroso del contenido de la ley hemos estado en todos los debates hemos planteado nuestras propias alternativas creo que hemos criticado de manera rigurosa puntos esenciales

hemos intentado de hecho alejarnos de frases hechas o de lugares comunes o incluso de posibles etiquetas que otros partidos políticos han utilizado

más allá de que podamos coincidir con algún otro grupo en algunas críticas o con bastantes críticas o con más de algún grupo político efectivamente esto es así creo que hemos tratado de señalar en todo caso cuáles son nuestras razones para oponernos a esta ley creo que hemos hecho ya digo un estudio riguroso de la materia porque nos parece un asunto esencial

el sistema tiene graves problemas y la obligación de los representantes políticos es proponer reformas proponer cambios por lo tanto no hemos hecho en ningún caso ninguna caricatura hemos apuntado razones razones que son nuestras razones hemos dicho que esta ley no revisa el modelo pedagógico mantenido en el tiempo y por lo tanto no va a resolver los graves problemas que existen en el sistema educativo español hemos dicho que la lomce mantiene la existencia de diecisiete subsistemas autonómicos

con algunos cambios con lo cual es imposible en nuestra opinión que vaya a resolver los problemas que esa misma ley que la propia

en su justificación de ahí por cierto que no pensemos

como algún grupo plantea incluso a través de alguna propuesta de resolución hoy mismo o incluso como se llegó a plantear en el congreso de los diputados no pensamos que

sino que habría que aprobar una nueva ley

hay que aprobar una nueva ley ya digo nuestras razones

antepone conveniencias administrativas y convicciones de partido a criterios propiamente científicos y sociales la lomce no mejora la selección y la situación del profesorado

introduce la religión evaluable asumiendo como se ha dicho las reivindicaciones de la iglesia católica y de los sectores más conservadores del partido popular la lomce suprime educación para la ciudadanía

introduce la ambigua demanda social como criterio para programar la oferta educativa mediante el régimen de conciertos

relaja las exigencias y el control a los centros privados concertados la lomce introduce la separación por sexos subvencionada

rebaja la autonomía de los centros en fin entre otras muchas razones estas son por lo tanto nuestras razones otros pueden tener otras

estas son las nuestras por eso décimos que esta ley no sirve para resolver los problemas que tiene la educación en españa y por eso décimos que esta ley es una oportunidad perdida es ciertamente curioso que

explica en su justificación los problemas existentes o al menos algunos de ellos o bastante de ellos los problemas existentes en el sistema educativo

los llega a señalar pero sin embargo no introduce medidas para resolverlos incluso introduce problemas nuevos algunos de los cuales ya he apuntado

y nosotros pensamos que se trataría de hacer justo lo contrario mantener los elementos positivos del sistema educativo español elementos positivos que efectivamente existen pero

existen y son cuantiosos y por esto hace falta una nueva ley porque nosotros sí pensamos que hacía y hace falta una nueva ley no esta

las diferencias entre comunidades autónomas tal como se ha dicho en los últimos tiempos se han mantenido en el tiempo lo cual indica que la anterior ley no resolvió

siguen sin progresar y las diferencias se mantienen por lo tanto es una nueva evidencia otra evidencia de que había que reformar nosotros reclamamos una ley educativa que ataje y resuelva los problemas educativos existentes

en su conjunto y que corrija también los problemas existentes en euskadi una ley educativa que supere las luchas partidarias y que piense realmente

una ley educativa con amplio consenso y con vocación de durar al menos dos décadas veinticinco años treinta años ese debería ser el objetivo

de hacer esto una ley educativa progresista

una ley coherente para todo el país una ley educativa basada en los principios éticos y políticos comunes a todos los ciudadanos

lugar de residencia o creencias religiosas o ideológicas una ley educativa que configure un sistema educativo en todo el estado y que impida la instrumentalización de la enseñanza al servicio de determinados nacionalismos cosa que ha ocurrido en españa en los últimos años y también aquí en euskadi en fin este es nuestro

alternativo que esperamos pueda ser posible en cuanto upyd pueda condicionar al gobierno de españa que espero pueda ser pronto

ningún compromiso para derogar esta ley con grupos con los que no compartimos qué es lo que debe hacerse en el futuro o con grupos que piensan que todo

peores vamos a defender así lo hemos hecho nuestro propio proyecto alternativo con nuestras propias razones con nuestros propios argumentos para alcanzar objetivos señalados atajar los problemas de la educación fracaso escolar abandono temprano

tener un sistema más eficaz para promocionar el talento para prestigiar la formación profesional para introducir una mayor competencia entre centros para mejorar la cualificación del profesorado la empleabilidad de los jóvenes para conseguir el mejor desarrollo humano también de nuestros jóvenes para garantizar la autonomía de los centros en fin estos son nuestros objetivos estas son las razones por las cuales nosotros rechazamos las razones que explican por qué hemos sido tan críticos durante todos estos meses en relación a este proyecto educativo que no resuelve los problemas fundamentales que tiene el país y que incluso crea problemas nuevos esto es lo que después trataremos de recoger en las propuestas de resolución que plantearemos nada más y gracias

bien efectivamente me toca volver a defender la lomce en solitario

nosotros nos cuestionábamos cuál era el sentido habíamos tenido la oportunidad ya de debatir sobre la lomce en comisión en esta cámara

donde se aprueba esta ley en la que todos ustedes

en las cortes generales han tenido la oportunidad de exponer su posición

hoy se trataba de repetir las posiciones aquí por qué pues porque

a una especie de carrera para ver quién se opone más

a ver quién hace más meritos en la oposición entre bildu y el pnv entre el partido socialista que le dice oiga usted cuándo lo va a recurrir

y semanas asistiendo a esta especie de pelea por a ver quién saca más pecho

aquí en el país vasco no yo creo que no tenía otro objetivo

pleno monográfico que buscar efectivamente esa pelea para ver quién se muestra más beligerante

bien cada uno ha venido a justificar su posición en concreto la consejera que ha intervenido ha tratado de justificar su posición la posición del gobierno un relato de los hechos que ya conocíamos había tenido la oportunidad de exponerlo ya también en la cámara

esa carrera de méritos para tratar de justificar

a recurrir esta ley nos dice que va a recurrir la ley nos habla

sospecha tiene indicios suficientes para creer que efectivamente aquí se vulneran preceptos constitucionales nosotros vamos a estar muy ansiosos por conocer cuál es la respuesta del tribunal constitucional porque estamos convencidos de que se ha sido especialmente escrupuloso

con las competencias de las comunidades autónomas desde el principio sin conocer

ya se anunciaban recursos por eso el gobierno ha sido especialmente

y escrupuloso con esas competencias en relación con la definición de los contenidos y también con los criterios de evaluación se trata

y también se las reconoce la constitución la constitución reconoce competencias a las comunidades autónomas y aquí tenemos capacidades plenas en materia educativa pero también

y eso el estado ha decidido en esta ocasión

el gobierno pretende ejercer la propia responsabilidad aquella que le otorga la constitución se habla de un exceso ilegítimo

en todo caso lo que queremos defender es que

en aquellas materias en las que tiene que ejercer también

responsabilidad a la hora de dar coherencia al sistema educativo efectivamente

estamos evaluando una ley para modificar y para mejorar el sistema educativo en españa estamos hablando del marco luego cada comunidad autónoma va a tener

para tomar sus propias decisiones dentro de ese marco claro que sí pero nosotros tenemos que pensar en cuáles son los problemas generales que tiene el sistema educativo en españa no pensar como aquí estamos por encima de la media

es que ustedes cuando planteen una ley como lo que nos anuncia una ley de educación para el país vasco no va a tener ninguna referencia relación con los centros que obtienen mejores resultados

que su ley no va con nosotros que nosotros ya estamos por encima de la media

las leyes tratan de abordar los problemas del cauce central de la educación y en este caso del cauce central de la educación en españa vamos a hablar de algunos datos

el abandono educativo temprano en españa es del veinticinco por ciento en europa

a más a más si seguramente estos instrumentos nos van a permitir

el paro juvenil españa cincuenta y cinco coma seis por ciento la media en la unión europea es el veintitrés por ciento entre los jóvenes entre quince y veinticuatro años los titulados de secundaria

de que euskadi está en la media europea de la ocde alrededor del ochenta por ciento

muy poco por encima del sesenta por ciento y esos datos hay que mejorarlos hablaba de la población

la media de la ocde era del quince coma ocho por ciento parecido nosotros estamos en esas medias

a las regiones europeas más ricas nosotros en muchos indicadores estamos a la cabeza de europa

en la media pero es que españa no está en la media el conjunto de la media española dice que la población que en españa ni estudia ni trabaja es del veintitrés coma siete por ciento frente a esa media europea del quince

según los informes pisa etcétera nos dicen que en españa los alumnos

que mejorar y sobre todo hablaba de las diferencias entre comunidades autónomas el informe de la unión europea dice que españa es el país con mayores diferencias entre sus comunidades autónomas entre sus regiones en los resultados académicos eso es algo que se debe corregir

la igualdad de oportunidades se defiende tratando tratando de incorporar instrumentos para aquellos que están por debajo de la media puedan incorporarse también y es verdad que nada de lo que viene en la lomce trata de imponer y de modificar nada y yo creo que hay que desmontar algunas falsedades en relación con la lomce en relación con la

ya le gustaría le parece muy poco no no no recentraliza nada según el señor maneiro

mayor grado de autonomía a las administraciones educativas y a los centros educativos que ninguna ley anterior

de desarrollar y tomar nuestras propias decisiones muy fácil hablar de las leyes del franquismo aquí siempre

las leyes nos retrotrae al franquismo pero qué tonterías son estas hoy en el dos mil trece de que esta ley nos retrotrae al franquismo cuando esta ley todos los mecanismos que introduce de reforma son mecanismos que están en este momento funcionando en otros países de europa de nuestro entorno de la unión europea

el euskera relegado a tercera cuarta quinta por qué

en un momento en el que el euskera con el tratamiento que se le da de asignatura para la comunidad autónoma

íntegramente por la comunidad autónoma pero cuál es el tratamiento diferencial si el que unas asignaturas que se llamen troncales etcétera no significa que unas sean de primera y de segunda o de tercera

si lo que garantiza esta ley es que la enseñanza de las lenguas propias

del euskera queda reservada íntegramente al país vasco

ustedes qué es lo que están contando a quién quieren engañar

a diseñar la propia comunidad autónoma se segrega por la evaluación las pruebas de evaluación segregan nosotros creemos que la evaluación

que se obliga a financiar la educación diferenciada he oído por ahí no es verdad

educación diferenciada y cada comunidad autónoma va a decidir si la financia o no

cada comunidad autónoma decidirlo la capacidad está en cada una de las comunidades autónomas

aquí ha estado gobernando el partido socialista el partido nacionalista vasco y bildu la educación

por qué vienen con esta demagogia que ha estado gobernando euzko alkartasuna muchos años y se ha estado subvencionando la educación diferenciada entonces yo creo que

que hay que ir desmontando la señora celaá habla de la religión

y dice a ver si el papa francisco va a cambiar estas cosas oiga es que no tiene que ser el papa francisco quien cambie estas cosas nosotros

claro el gobierno las cortes los parlamentos para eso estamos para cambiarlas cuando gobernamos cuando gobiernan ustedes también pueden cambiarlas y no las han cambiado

pero qué dicen de la enseñanza de la religión la religión no tiene que ser cursada por nadie que no quiera hacerlo

y se considera un privilegio de las diferentes confesiones religiosas que se oferte la religión pues si se considera un privilegio de las confesiones religiosas habrá que cambiar los acuerdos que se tienen

no han cambiado ningún acuerdo y nosotros a través de la lomce lo que queremos respetar es la libertad de las familias la libertad de las familias libertad a algunos les chirría libertad de elegir

cuanto más mejor elegir itinerarios pero también elegir el proyecto educativo se dice además

que esta es una ley para apoyar la enseñanza concertada esta es una ley que privilegia a la enseñanza concertada bueno creo que están aquí algunos representantes aplaudiendo con las orejas

la mitad de nuestro sistema educativo esta es una ley que viene a reforzar y apoyar la enseñanza concertada nos lo dice quien

abarca solo al veinticinco por ciento esta lomce esta ley

a defender los proyectos educativos para que las familias puedan elegir en las mejores condiciones de transparencia

es la mejor manera también de defender la enseñanza pública porque los servicios públicos termino ya señora presidenta no se están poniendo en riesgo ahora por quienes quieren modificar las leyes para garantizarlos

que gestionan mal los recursos públicos aquellos que gastan los que no tienen aquellos que

aquellos que ponen en riesgo y arruinan un país aquellos son los que

señora arrondo cuando esta

modificó el curriculum lo hizo para introducir para completar educación para la ciudadanía en una dirección absolutamente apoyada por la comunidad escolar con

para las víctimas para dar seguridad jurídica al euskera que pasó de lengua principal cuestionada

a lengua de atención preferente como usted bien conoce y efectivamente haciendo que se dieran muchos pasos para la mejora del euskera como por ejemplo introducirlo en los centros extranjeros cosa que de mis predecesores nadie hizo pero le voy a decir en atención a mi compañero de escaño le voy a decir que

quiere traer aquí datos hablamos de los datos pero para hacer afirmaciones que no se sostienen sobre los datos su versión

y también le voy a decir otra cosa señora arrondo porque usted también está

pero está criticando al gobierno sobre texto de falta de realismo y le voy a decir que la persona que más

y su grupo y le voy a decir por qué porque mire no solo en madrid habrá una ley sino en bruselas europa federal

alemanes para muchas cosas porque aquí podríamos hacer muchas más cosas y de mejor manera por lo tanto si usted me dibuja un escenario

que no tiene este país usted no está en la realidad

hablamos aquí de la realidad guste o no guste por lo tanto no en madrid la ley en bruselas porque lo que estamos tratando de hacer

a toda la educación porque entre otras razones nos gusta queremos que el titulado aquí

en londres en bruselas y en cualquier otro lugar esas son las razones con respecto al señor maneiro y al señor

señor maneiro el sistema productivo español ha trabajado y ha funcionado como el

de tal manera que cuando había mucho turismo y mucha construcción se llevaba a los niños del sistema educativo

la oferta del sistema productivo se cierra se va a producir el efecto contrario es decir habrá más gente no por la ley wert sino porque como no hay oferta productiva en el mercado habrá

en el sistema educativo por eso el sistema educativo tiene que abrir las puertas no cerrarlas y fíjese usted como están los datos esto también para el señor oyarzabal

o se quiere ignorar que aquí hubo cuarenta años de franquismo en los cuales los intelectuales no no perdón perdón si le voy a dar datos

y se tuvieron que marchar y eso ha venido gravitando en la mochila española durante mucho mucho mucho tiempo sabe usted

un cincuenta y siete coma cuatro por ciento de la población española tenía solo estudios primarios

estudios primarios fíjese usted lo que le estoy diciendo en mil novecientos setenta y cinco existía un diez por ciento de niños de seis a once años que no estaban escolarizados usted ha mencionado antes a austria y me he tomado la molestia de buscarla austria que usted ha mencionado como un ejemplo

paradigma fíjese usted cómo está si está de pena oiga austria

tiene una separación de niños y niñas a los diez años pero sabe usted lo que consigue en pisa oiga si es que es una cosa ya se lo he dicho antes alemania

sabe usted cuánto ha conseguido españa cuatrocientos ochenta y uno además

que hablemos de españa también no lo hemos traído nosotros por lo tanto mire usted finlandia mire usted suecia mire usted noruega dieciséis años pero sabe usted lo que proponen ustedes si es que lo que ustedes proponen es que nada menos en segundo

ya las autoridades educativas den un aviso a la familia para decirle oiga que el niño no va bien y en tercero de la eso ustedes empiezan con tres nada menos opciones la opción por así decirlo la de los más listos la opción un poquito tal y la opción de formación profesional inicial no sé exactamente cómo les llama pero lo tenía por aquí porque mientras usted hablaba lo he buscado

realmente lo que ustedes están haciendo es una segregación en toda línea que afecta a la vida de la persona afecta a la vida de la persona y eso es ir en contra no solamente

ningún niño en plena adolescencia en plena pubertad

semejante suerte tiene que llevar el recorrido general y más le voy a decir es decir había una ley de consenso que ustedes estuvieron a punto de apoyar hasta que

como les daba a ganar ustedes la echaron a la papelera pero le voy a decir también que realmente es muy difícil

las orientaciones de las evaluaciones internacionales hablan precisamente de mejorar e impulsar políticas tales como disminución de ratios aumento de la diversificación aumento del profesorado

porque esta ley además no tiene ninguna memoria económica tiene una memoria económica vamos que es

un canto a la alegría porque ciertamente cuando han arrebatado del sistema

entonces ya me dirá usted como puede casar una educación que necesita recursos para desarrollarse en lenguas en nuevas tecnologías en igualdad en diversificación con estos recursos

esta ley copia miméticamente lo que ustedes han venido haciendo en madrid

se lo diré de otra manera lo que hacía en madrid esperanza aguirre ha sido la base fundante para

de centros son los que producen la desigualdad porque lo que tiene que medir un centro educativo es el valor añadido no se puede

y por lo tanto va a ser el centro el que elijan a los alumnos con lo cual produce una desigualdad tremenda sin embargo el que no tiene nada tendrá que ir al que quede vacío eso inaceptable y eso está pasando por eso décimos entre otras cosas

que respetamos enormemente la oferta que hace la educación concertada que la respetamos y que la queremos mantener pero siempre el referente de una administración pública ha de ser obviamente la red pública la educación pública esa es su primera obligación porque la concertada hoy está y no tienen obligación de seguir mañana pero la educación pública tiene que

con respecto a la señora consejera pues mire señora consejera la verdad francamente no puedo comprender que usted

a los anteriores supuestamente de lo contrario no lo puedo entender

un año después de que ya estábamos nosotros planteando propuestas

que la comisión general y en la conferencia sectorial este grupo el gobierno del lópez no planteaba propuestas alternativas

y a todos los demás naturalmente y habíamos trabajado muchísimo y sabe usted dónde habían ido todas las propuestas al mismo sitio que las que usted ha hecho

pero usted por un principio de respeto a los antecesores por un principio de continuidad de la administración que es mucho más importante tenía que haber retomado

allí donde habían sido dejados y si usted por lo que sea considera que es mucho mejor decirle al señor wert oiga vamos a ver si podemos volver a hablar pero lo que de ninguna manera usted hizo y desde luego con ninguna firmeza es primero dijo que iba a abrir un diálogo sobre qué señora si esto es intrínsicamente malo

luego una moratoria oiga señora una moratoria cómo una moratoria lo que es malo para mí es malo para los demás y además una moratoria significa claudicar ceder porque lo que usted le está diciendo es le compro la mayor pero vaya usted un poquito más atrás en el tiempo y eso es lo que usted hizo y a mí eso

ni siquiera respetuoso con lo anterior usted partió de una posición haranista y usted y además me va a decir otra cosa porque casi no tengo tiempo me va a decir usted

porque claro si usted piensa que el sistema educativo vasco tiene todas las competencias oiga entonces quién teme a virginia woolf oiga siga esperando usted a godot a ver si llega quiero decirle heziberri dos mil veinte tiene dos problemas

es que si quiere mantener a todo lo que significa la educación vasca conjuntada tiene usted que quitar determinados tics que solo pertenecen a una parte

por mucho recorrido que tenga será un decreto y un decreto señora mía no puede nunca contra la ley orgánica por tanto qué queda

quedan dos formas una la insumisión que yo la considero no realista y que además a usted la volverían loca con recursos y no sabría por dónde salir un gobierno se debe al principio de legalidad y queda la otra

que es el recurso incluso ante el tribunal supremo que es la suspensión la petición de suspensión cautelar

ir ganando tiempo con inteligencia en el ejercicio de sus responsabilidades para evitar aquello que usted considere nocivo para el sistema educativo
vasco celaá anderea amaitzen joan y así llegar al momento puntual

porque la perderán la mayoría absoluta porque
la perderán y pronto y llegaremos aquí eskerrik asko

bai eskerrik asko legebiltzarburua señor oyarzabal por mucho que usted le defienda

la pedagogía y la educación no van con él tiende a la improvisación constante le sobran actitudes prepotentes

es insensible ante el clamor popular ese que usted defiende es josé ignacio wert el ministro que predica valores que él no practica el diálogo la colaboración la innovación no hay ni rastro de ellos en su conducta vuelvo a reiterar que no negamos la posibilidad de mejorar nuestro sistema estamos dispuestos a trabajar en ese sentido pero en ningún caso

el propio ministro reconoció en las cortes que el sistema educativo vasco es bueno incluso muy bueno por tanto cómo es posible que pretenda aplicarnos las mismas medidas que a comunidades con realidades totalmente distintas a las nuestras

intento de homogeneización ya se lo he dicho porque la necesidad de guardar coherencia

como decía un profesor universitario vasco el día pasado el estado está utilizando el mecanismo de la red pelágica el mecanismo

en educación y en todo lo que se les pone por delante

el gobierno vasco pero sí le voy a decir una cosa y es que los socialistas vascos en el congreso y en el senado no han sido muy responsables porque ante la oportunidad de votar en favor

que pretendían que el sistema educativo vasco pudiese seguir desarrollándose como hasta ahora ustedes los socialistas vascos han votado en contra y una comunidad unida en torno a un proyecto pedagógico y su no es mentira señor pastor puede usted acudir a las actas

una comunidad unida en torno a un proyecto pedagógico y su consiguiente desarrollo curricular en forma de decreto puede tener un amplio recorrido y el trabajo sin duda va a ser válido

porque va a constituir una base sólida para acordar una nueva ley en cambio una ley aún siendo orgánica si no cuenta con la aceptación de la comunidad política ni de la comunidad educativa está abocado al más rotundo fracaso

actitud para el acuerdo e iniciativas con consenso eta arrondo andreak aipatu du euzko alderdi jeltzalearen jarrera

izan daitezen ahí está la clave antes de tomar cualquier decisión hay que prever y valorar bien las consecuencias que puede tener y el partido nacionalista vasco lo tiene muy claro

hezkuntza sistema osoak aurrera egin dezan trataremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para esquivar la aplicación de la ley

pero sobre todo y en todos los casos lo haremos sin poner en riesgo al alumnado al profesorado

no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación compleja como esta

desde parámetros de seguridad jurídica como hemos hecho en otras ocasiones estamos seguros y seguras de que el gobierno vasco seguirá ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía y de que seguiremos dando pasos hacia un sistema educativo excelente y señor oyarzabal dice que

la apoya la mayoría de los españoles pero nosotros a lo que dice la sociedad vasca que es a la que usted debería de mirar

un solo momento a mirar a euskadi y ver lo que le está diciendo a la sociedad vasca señor oyarzabal la sociedad vasca le está diciendo a usted y a todos sus compañeros algo que miguel unamuno ya dijo